andeka larrea larrondo vanessa rodríguez fontaneda rafael romero pozo concha arechaga iturregui

rosa miren pagola petrirena alfonso arejita

gracias señora presidenta señores y señoras parlamentarios señora ubera

cuidadosamente su moción y habíamos pensado hacer alguna enmienda en puntos que pudiéramos no estar de acuerdo pero el problema con la moción que nos trae usted aquí es que toca infinidad de puntos infinidad es cierto que podemos coincidir

muy preocupante pero también es cierto que como dijo la consejera estamos en un nuevo paradigma para la educación

nosotros vemos que ustedes piden un diagnóstico

los diagnósticos hay que hacerlos claro que sí pero los diagnósticos se contrastan para saber si se va por el buen camino o por el mal camino con el objetivo que se persigue

es que el objetivo que perseguimos me parece que nuestro grupo y el suyo no están de acuerdo nosotros en ese nuevo paradigma aspiramos a un nuevo modelo a un nuevo modelo porque este modelo ha fracasado

sino en las mismas evaluaciones que va haciendo la consejería es decir necesitamos un cambio de modelo y creemos que cuando la consejera se refiere

que hay un nuevo paradigma pues aunque algunos

difícil de oír prácticamente estamos diciendo lo mismo entonces nosotros creemos que el diagnóstico que ustedes proponen si no se propone un nuevo paradigma y en nuestras palabras un nuevo modelo para contrastar con él

necesitamos primero establecer ese nuevo modelo o ese nuevo paradigma para poder saber en ese diagnóstico

luego ustedes hablan de recuperar y ampliar el programa solidario de libros de texto nosotros con eso no estamos de acuerdo

si no recuerdo mal este programa consiste en que

los libros duran cuatro años son adquiridos por la consejería

a nosotros nos parece que es un modelo fracasado porque claro que paguen lo mismo el que estrena el libro que el que lo coge al cuarto año bastante

perjudicado ya no es un modelo que funcione además es que nos parece

aquí falta el contrastar con otras instituciones qué se está haciendo hay muchos ayuntamientos en euskadi muchos que ya han abordado el tema de los libros y sobre todos lo han abordado desde donde hay que abordarlo desde el punto de vista de renta entonces según la renta de las familias las familias tienen subvenciones para adquirir esos libros nuevos

lo que no nos puede pasar es que en un mismo tema haya dos o tres administraciones todos actuando de una forma diferente

desperdiciar dinero y no estamos para eso no estamos para eso y además el mismo concepto de los libros nos parece

y yo lo siento por todas las empresas editoriales etcétera etcétera yo creo que los libros cada vez se van a usar menos no solamente vamos a pasar al formato digital utilizando internet sino incluso al formato digital

entonces antes de meternos en estos gastos que como digo hay otras administraciones en euskadi

hagamos una reflexión sobre ese cambio de paradigma

en el tercer punto ustedes hablan del personal nos parece un poco raro que en el punto primero pidan un diagnóstico sobre personal y en el tercero ya hayan sacado las conclusiones

esperemos a que se haga ese diagnóstico para fijar

desde luego estamos de acuerdo en que la tasa de precariedad es inaceptable y habrá que trabajar en ello estamos de acuerdo en que la tasa de reposición tiene que ser la adecuada que no vale con sustituir los que se jubilan sino que además hay que atender a otros criterios para que la tasa de reposición sea efectiva pero mire los números que ustedes nos traen están calcados de los que pedía

en la comisión de educación de ayer los sindicatos ela steilas y lab son calcados es lo mismo

es la que presentaron y yo quiero recordarle cómo en esa comisión de educación estos sindicatos pedían una educación no ideologizada y cuando yo misma les dije que si había algo ideologizado era la propuesta que ellos traían

admitieron que era cierto y tienen todo el derecho a tener una ideología propia todo el derecho pero lo que no tienen es el derecho de imponérnoslo a todos es que no tienen ese derecho

vamos a votar en contra primero nos hubiera gustado que estos temas se hubieran analizado uno por uno porque aquí

y nos hubiera gustado que hubiéramos analizado uno por uno primero la precariedad

y luego un diagnóstico contrastado para saber si vamos bien o mal con un nuevo paradigma porque mire al final sabe qué impresión nos queda que ustedes quieren hacer lo mismo

con más dinero y saben cuál es nuestra postura hacer más y mejor con el mismo dinero

hacer lo mismo pero gastando más o hacer más y mejor gastando lo mismo eso no quiere decir que nosotros nos opongamos

en capítulos definidos pero sí que creemos que hay que redistribuir el gasto hay que redistribuirlo de otra forma y

es un treinta por ciento superior a la media del resto de comunidades españolas

claro que pese a ese gasto tan tan tan superior nuestros resultados son inferiores al resto de comunidades

definir ese nuevo paradigma una vez que lo definamos sí tendremos que hacer un diagnóstico para ver si nos acercamos a él o no y en tercer lugar

y para hacerlo mejor pero con un gasto con el que otras comunidades y con mucho menos han demostrado que se puede hacer así
más y mejor muchas gracias eskerrik asko bengoechea andrea

gracias presidenta en el grupo socialista nos preocupa la calidad del sistema educativo nos preocupa y siempre nos ha preocupado pero
señora ubera he de decirle que no vamos a apoyar su propuesta y su moción

pero entendemos que se ha equivocado usted de instrumento quizás ha pecado de exceso de voluntarismo

concebir que se confunda el contenido con la forma y nos parece también que no es la forma correcta de plantear todas estas medidas este sinfín de medidas

iniciativas especificas para tratar algunos de los temas que usted plantea en la moción algunas de las cuales o varias están atascadas en la comisión de educación

entendemos que la educación es un ámbito muy importante demasiado importante para la sociedad y me imagino que en eso estaremos de acuerdo pero para ello hay que trabajar las cosas con un sentido integral y más a fondo no votar una especie de miscelánea de medidas a la vez cuando cada una

para la mejora de la educación podemos estar de acuerdo con lo que ustedes plantean en su moción con matices evidentemente nosotros pusimos en vigor por ejemplo el programa solidario de libros de texto creo que es importante recordarlo y consideramos además que realizar diagnósticos siempre es bueno

tenemos ofertas públicas de empleo y ahí es donde se debiera atajar el problema de la eventualidad hacer un plan que garantice los mecanismos necesarios

y dar estabilidad tanto al personal docente como a los centros escolares y a los alumnos

donde entre todos podamos llegar a un acuerdo en común para solventar ese problema pero no se trata solamente de evaluar mediante diagnósticos

con mucho rigor eso debe ser una tarea de todos la de mejorar el sistema educativo y hay que hacerlo de forma en la que podamos participar todos y estoy diciendo cosas muy parecidas a las que dije en esta misma tribuna cuando analizamos

un informe que ya nos da un cierto diagnóstico de cómo estaba la situación

en un tótem pero algunas veces ese informe se ha usado

entre países o entre comunidades autónomas a ver quién es mejor y nos gustaría resaltar algunos elementos que a nosotros sí nos parece que inciden directamente en una escuela

itinerarios adaptados a cada colectivo estudiante evitar la concentración de estudiantes repetidores o clasificarlos en virtud de sus mejores o peores notas mejorar la autonomía educativa de cada centro o mejorar las condiciones del personal docente de cada centro reduciendo la eventualidad

pero en este contexto y aludiendo a su iniciativa hay una serie de aspectos que nos parecen importantes relacionados con los procesos de selección

un segundo aspecto que se refiere a la responsabilidad de los centros a darles una mayor responsabilidad a los procesos educativos una tercera relacionada con la gestión propia de los recursos por parte de los centros y una última relacionada con la relación

y de la influencia de que se fomente un buen clima en el aula en cada colegio consideramos que los centros que ejercen su autonomía de mejor manera

obtienen mejores resultados independientemente del nivel económico de los centros o incluso del origen de los alumnos que exista en cada uno de los centros y en el apartado de los recursos si lo comparamos con el resto de comunidades autónomas no podemos quejarnos por lo tanto

un problema de recursos nuestro sistema educativo afortunadamente tiene una privilegiada financiación y no se ha visto sometido a los recortes sufridos en el resto de autonomías

desvela debilidades sobre el sistema educativo vasco

la mayor inversión por alumno de toda españa y otra cosa

para sacarles el máximo rendimiento posible para nosotros usar de forma correcta y eficiente los recursos de que disponemos es muy importante diría yo que primordial y hay que contar con los recursos necesarios destinados a aquellos centros públicos

de perfil socio económico más bajo y con alumnado en riesgo de exclusión para que contribuyan a compensar las carencias y a garantizar el pleno desarrollo del alumnado y defendemos también que determinados colectivos tengan su debida asignación presupuestaria un alumnado con necesidades educativas especiales

o aquellos alumnos con idioma distinto al vehicular del centro y en relación con las plantillas de las que hablan ustedes también en su iniciativa en los próximos años se alcanzarán previsiblemente unas tasas de jubilación importantes y en consecuencia la incorporación al sistema educativo vasco de nuevos profesionales se necesitan nuevos perfiles docentes que se encarguen de avanzar en el trilingüismo de aplicar las tic las tecnologías de la información

a los centros educativos y el acuerdo de gobierno que hemos suscrito dedica un apartado especial a la formación y a la estabilidad del profesorado con aumento de personal con la implantación de un nuevo modelo de formación del profesorado enmarcado en el contexto europeo

y con un incremento de los recursos personales especializados en la atención a la diversidad por ello reitero que nos parece muy bien que se propongan iniciativas para la mejora del sistema educativo que no solo se basen en los recortes

de otra manera distinta de la que ustedes han hecho porque sabemos que la educación debe de ser entendida como una inversión de futuro para generar desarrollo económico y bienestar social y sabemos que invertir en educación es hacerlo también en cohesión social y en competitividad coincidimos con ustedes en ese aspecto

pone sobre la mesa que hay que establecer objetivos de mejora más ambiciosos es verdad de cara al dos mil veinte y entre todos por eso mismo debiéramos de encontrar

un suelo común no solo que solucione problemas puntuales y específicos como los que hoy se plantean o los que se puedan detectar a través del informe pisa u otros informes sino para poner en marcha un gran pacto educativo

con el mayor consenso posible y a eso les queremos emplazar a ustedes con el concurso de todos los partidos políticos porque es la forma de hacer educación

un elemento imprescindible para el desarrollo y el crecimiento de un país y por eso tenemos que convertir la educación en un conjunto de medidas con el más amplio consenso posible

en definitiva la calidad de una educación integral se consigue sobre la base de un proyecto de futuro no poniendo parches puntuales a los problemas que vayan surgiendo en cada momento por ello queremos impulsar un modelo de educación integral adecuado a la ciudadanía vasca

en la que combine la cultura científica y las humanidades que se complete con las artes y el deporte y se dote al alumnado de una visión crítica y transformadora de la realidad y todo eso debiera de sustentarse

fruto de un gran pacto educativo consensuado e integrador y que dé respuesta a las demandas y necesidades de una sociedad que está y va a seguir estando en constante cambio y el gobierno vasco debe de impulsar ese debate un debate en el que tanto esta iniciativa que tratamos hoy como las futuras que se pueden debatir

y se abra un debate sobre la necesidad de ese pacto de ley contando no solo con los grupos de esta cámara con todos los agentes a fin de garantizar el derecho del alumnado
a recibir una educación de calidad muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

politikoa behar da elkarrekin podemos nace para ser herramienta de transformación social que tiene como una de las señas de identidad más reconocidas

y que impulse una ciudadanía crítica activa y partícipe de su futuro la participación debe ser una seña de identidad de la educación vasca la pregunta es se están realizando políticas educativas de la mano de la comunidad educativa se está escuchando desde la administración sus demandas

de los tantos planes que se diseñan qué tipo de procesos de participación se ponen en marcha desde el departamento de educación la realidad es que nos encontramos en un mes de marzo en el que vivimos la convocatoria de dos huelgas dos huelgas generales de la enseñanza

mareas por educación pública muchas organizaciones colectivos y plataformas y que fue apoyada por los sindicatos comisiones obreras y ugt y la otra la tenemos la semana que viene

creo que la mayoría de quienes estamos hoy aquí conocemos de sobra los motivos de la huelga y las movilizaciones pero por si acaso lo recordamos

y rechazo a heziberri dos mil veinte leyes que están siendo elaboradas sin contar con la participación de la comunidad educativa

a golpe de boletín y de decreto movilizaciones para pedir el compromiso de no realizar más recortes en educación para recuperar los recursos humanos y materiales que se han perdido para revisar las condiciones laborales de las plantillas para acabar con las altas tasas de eventualidad

ratios ope la externalización de los servicios y un largo etcétera

una muestra clara de que existe un gran rechazo y hartazgo por parte de la comunidad educativa respecto a la manera en que se están desarrollando las políticas educativas qué ocurre

giza baliabide gehiago eta hezkuntza komunitatearen komunikazio iraunkorra por otro lado un aspecto que claramente influye en la calidad de la educación es el desequilibrio o en nuestro caso equilibrio entre redes educativas

nos encontramos con un sistema educativo sustentado en dos redes que pretenden ser vendidas como complementarias pero que persisten en la segregación segregación escolar que en el caso de algunos centros es marginalidad como dijimos en la comisión de educación del lunes cuando la consejera de educación cristina uriarte nos presentó el segundo plan de atención al inmigrante ya con el primer plan dos mil doce dos mil quince

etapas redes y modelos lingüísticos estaba proporcionando una alta concentración de alumnado procedente de entornos desfavorecidos con determinados perfiles socio demográficos y pertenecientes a familias de bajo índice social económico y cultural

en determinados centros centros curiosamente y mayoritariamente de la red pública y el modelo lingüístico a mientras esta situación no cambie la escuela vasca seguirá contribuyendo a perpetuar las diferencias sociales y no lo décimos solo nosotros lo dice la plataforma a favor de la escuela pública vasca en gasteiz la asociación de padres y madres de euskal herria lo dice la ocde las separaciones diagnósticas y save de children entre otros

egonkortasuna bermatzea eta abar estas son algunas de las medidas que se pueden y deben

pero sobre todo hay que mejorar y reforzar el sistema público educativo es muy sencillo con dinero público escuela pública y es que nos seguimos preguntando si de verdad compartimos el significado de servicio público porque garantizar la igualdad de oportunidades

para todos y todas por igual lo que no podemos permitir es que la escuela pública se convierta en subsidiaria de la privada subvencionada sin embargo basta con revisar los presupuestos del dos mil diecisiete y pensar realmente

en primer lugar yo quiero romper una lanza por la dignidad de todos los que estamos aquí

pero quiero recordar que cuando se dice los políticos y la comunidad educativa vamos a ver quiero recordar que nosotros somos la gente somos el cuerpo más

estamos oyendo aquí cómo mucha gente dice que habla en nombre de la comunidad educativa desde luego existe una comunidad educativa no hay duda plural diversa

de la que nadie puede hacerse portavoz y si alguien pudiera hacerse portavoz sería el cuerpo político que ha sido elegido en unas elecciones a mí esto me parece importantísimo porque es que este discurso

y yo quiero romper una lanza a favor de este cuerpo político eso para mí es importantísimo entonces somos los representantes de la gente y somos los más legitimados vamos ahora a algunas otras cosas que se han dicho aquí hemos oído aquí hemengo hezkuntza da

bueno nosotros creemos que la política se hace de hoy para mañana no se puede hacer política mirando para atrás

entonces yo no creo que en estos momentos la educación pública de euskadi sea

igual que nosotros somos muy críticos con la situación también tenemos que decir que las tasas de abandono y las tasas de fracaso escolar

son bastante menores que en otros sitios pero lo que no hay duda es que como oposición aquí estamos para decir lo que falta como oposición y como gente padres madres y

entonces con la moción que nos ha traído la señora ubera ha habido algo curioso y es que prácticamente todos los grupos han

en que en gran cantidad de las cosas que ha dicho son para reflexionar y sin o para darle la razón en las soluciones que proponen sí que es algo en lo que hay que evolucionar y hay que cambiar en eso hemos estado todos de acuerdo esa es la base de una pacto educativo un pacto educativo hecho por

a la que nosotros legítimamente representamos y escuchando

pero señora ubera es lo más positivo que yo creo que saco de este punto de hoy el hecho de que todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar muchas cosas

está deseando participar en los foros en los que se hable de ese pacto educativo que creemos que tenemos mucho que aportar que desde luego nuestra perspectiva es global nosotros entendemos que toda la educación de euskadi subvencionada con fondos públicos responde a la libertad de elección de los padres de qué centro eligen

no va a ser contra nadie ni contra la escuela pública ni contra la escuela concertada todos los centros financiados por el erario público por todos los ciudadanos son para que la gente pueda elegir y que eso no es ningún dislate demuestra

que hay en euskadi eligen la concertada mientras que la otra mitad elige la pública pero nosotros vamos a estar allí en ese foro donde se discuta un posible futuro pacto por la educación vamos a estar sabiendo que construimos el futuro echarnos a la cara rencores del pasado vamos a estar sabiendo que no es verdad

todas aquellas cosas en la que nosotros creemos que debemos cambiar intentando aplicar ese nuevo paradigma y porque es nuestra obligación señalando las grandes posibilidades de mejora que tenemos ahí estaremos

porque nos parece que atentar contra la universidad es atentar contra la inteligencia contra el pensamiento crítico

que representa una sociedad civilizada respecto al punto que nos

yo como no dudo de su compromiso con la educación en este país ni con su compromiso por alcanzar un gran acuerdo quiero apelar a esa voluntad

creemos que era un conjunto de cosas no digo desconexionadas pero que no se pueden despachar

con una discusión de una hora en este parlamento y respecto al tema de los recursos que ha salido aquí lo hemos sacado nosotros también a nosotros nos parece que no es simplemente que nosotros reclamemos que pueda haber más recursos

a nosotros siempre nos parecerá insuficiente el presupuesto que se destine

nos parece importante que seamos capaces de gestionar con eficiencia esos recursos porque puede haber muchos y dilapidarse de forma poco conveniente para el sistema educativo y las comparaciones que se hacen con otros es decir es bueno es que

pero otros están peor yo creo que esa comparación no sirve ni se puede hacer yo no quiero compararme

en este país por lo tanto yo le agradezco mucho que usted haya dado la oportunidad a este parlamento de que vuelva a debatir ahí sobre temas

interesante pero me parece más interesante aún hacer un llamamiento a usted y a todos los grupos parlamentarios

contar con ellos para que seamos capaces tengamos la suficiente inteligencia el sentido común

para con una mirada larga ser capaces de cuajar un nuevo modelo educativo vasco a través de una ley que nos dé garantía de continuidad en los próximos años no quisiera que entrásemos en la espiral en la que hemos estado instalados en el resto de españa

de generación en generación y que creo que es un mal ejemplo y tenemos ejemplos en el resto de europa donde la educación es uno de los pactos básicos de país que son capaces de poner en marcha los países más avanzados de europa y en eso sí quiero yo
parecerme a ellos eskerrik asko pastor jauna

bai mila esker a elkarrekin podemos nos preocupan los presupuestos dos mil diecisiete de manera en que

partido popular recoja un apoyo o potenciar la educación concertada y el inglés

porque señora bengoechea efectivamente estamos ante un nuevo paradigma un paradigma de la educación y el ámbito educativo necesita cambios estamos de acuerdo y no tengamos miedos en hacer esos cambios

sin miedos y no tengamos miedo a escuchar a toda la comunidad educativa para ello

primero hay que querer hacer hay que saber hacer para poder hacer y luego hagamos pero igual deberíamos aunar criterios antes y debatir

qué entendemos por inclusión por igualdad de oportunidades o por servicio público respecto al libro solidario le diré que no solo es heredar libros viejos el libro solidario también trabaja y se aprenden valores

material en clase es respetar el material que es de todos y ese valor se aprende con ese programa que para muchas familias era especial y muy importante porque hay familias que no pueden hacer frente a cuatrocientos euros iniciales en septiembre en libros de texto

con respecto a las ope nos preocupa sobre todo que el número de plazas de esas ope cubran la reposición de los profesores que se jubilan y tengamos un eventualidad

esta situación afecta desde luego a la calidad educativa y señora bengoechea en cuanto a elegir centro

de referencia dígame si es tan sencillo elegir centro y que

y para terminar consideramos que para poder afrontar los retos que tenemos por delante avanzar hacia la excelencia y sobre todo para poder solventar los problemas ante los que nos encontramos hoy

por lo que es necesario que dispongamos de un diagnóstico real de la situación desde elkarrekin podemos creemos que ha llegado el momento de replantear las bases del sistema

y participativos que consigan sacar el sistema educativo vasco de su obsolescencia

si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo mila esker eskerrik asko

bere hitzetan las situaciones de escasos recursos que pueden tener algunas pensiones en los ciudadanos y ciudadanas vascas

adecuada por parte de la renta de garantía de ingresos considero decía la consejera sinceramente que desde el sistema de garantía de ingresos y de inclusión social dotamos de dignidad a las personas beneficiarias que este sistema hace ya una aportación a la justicia social a la cohesión a la integración al desarrollo humanos y a los indicadores de una sociedad avanzada beraz

denon artean porque ante este escenario y sabedores de la situación competencial actual creemos que este gobierno puede

actuar con las herramientas que tiene en sus manos sin demora y esto es lo que proponemos hoy que se responda a esos miles de pensionistas que cobran pensiones de miseria después de toda una vida trabajando que este parlamento diga

que los y las pensionistas de este país tienen derecho a una pensión digna y que para ello hoy por hoy se puede trabajar se puede trabajar profundizando

están en nuestras manos sin renunciar y sin renunciar lo digo por supuesto como ya hemos dicho en este parlamento en otras ocasiones a un sistema propio de pensiones o a la gestión económica de la seguridad social que que no se nos olvide hace más de treinta años que debería estar aquí porque tenemos claro que el sistema de pensiones estatal hace aguas porque tenemos claro que el sistema estatal está en serio riesgo de empeorar a futuro si no se toman medidas de forma inmediata pero eso no puede ser obstáculo para actuar ya porque no podemos permitirnos que haya ni un solo pensionista en bizkaia gipuzkoa o araba

indigna pudiendo como podemos complementarla este gobierno ni debe escudarse en que ya llega a los que lo necesitan con el actual complemento o en que cuando se tenga la competencia de la seguridad social se hará lo que se deba

zer hobetzerik hoy por hoy podemos entre todos los grupos dejar negro sobre blanco el compromiso de este parlamento con los

se profundizará en la vía de complementar y dignificar las pensiones que se tomarán las medidas para llegar a más pensionistas que a día de hoy

esos complementos de manera que progresivamente lleguemos a lo indicado en la carta de los derechos sociales europea en definitiva hoy hoy este parlamento puede dar un gran paso en el camino de garantizar unas condiciones de vida dignas

utilizando para ello las herramientas que ya están en nuestras manos porque es posible porque es factible porque es realizable

eskerrik asko en primer lugar decir que nuestro grupo está de acuerdo con la moción que presenta el grupo proponente estamos de acuerdo en lo que proponen que sencillamente

que intentar arrancar al gobierno una mejora en las condiciones de las personas pensionistas de nuestra comunidad precisamente en aquellas personas

una transacción y nos ha presentado una transacción que nosotros hubiéramos firmado muy gustosamente porque estamos de acuerdo y recogía muchas de las cosas que proponíamos lógicamente no todas pero no lo hemos firmado por una razón porque creemos y constataremos ahora que aunque hubiesemos firmado esa transacción no iba a salir adelante porque hoy en un tema como este

la troika vasca el partido popular partido socialista y partido nacionalista vasco y por lo tanto como pensamos que no iba a salir a no ser que ahora

yo desde luego lo voy a intentar como pensábamos que no iba a salir pues creíamos más conveniente mantener nuestra enmienda y así poder hablar de todas las cosas que nosotros

los objetivos de la enmienda que hacía nuestro grupo son básicamente dos uno

era el intentar que esta cámara hoy tomase un posicionamiento claro inequívoco en defensa de un sistema público de pensiones

a los ataques ideológicos que el sistema público de pensiones ha venido sufriendo en la última década y un segundo objetivo más relacionado directamente con la moción inicial que era intentar arrancar del gobierno ese

de cara a los complementos de las personas pensionistas de nuestra comunidad el primero de los objetivos nos lo planteábamos precisamente a raíz del debate que hubo en esta cámara por la interpelación del grupo proponente porque aquí se habló

del sistema público de pensiones actual y se habló de las cuantías bajas de la mayoría de las pensiones tanto en el conjunto del estado

y a nosotros nos preocupan estas dos cosas nos preocupa la cuantía de las pensiones de las pensiones bajas que son mayoritarias tanto en el conjunto del estado como en euskadi y nos preocupa el debate de la situación del sistema público de pensiones lo que no vamos a aceptar

está en un mal momento no funciona y por lo tanto tenemos que dirigirnos hacia otro tipo de sistemas de pensiones privados de capitalización bien sea como sustitutorios del público o bien sea como complementario

que el sistema público pasa por un mal momento y que está debilitado lógicamente porque las cotizaciones han disminuido hemos tenido tasas de paro

las condiciones de trabajo por lo tanto de cotización de las y los trabajadores pero pensamos también que porque las medidas políticas que se han tomado estos años

han acompañado esto de manera deliberada porque lo que buscan precisamente

a las compañías privadas que se dedican a estas cuestiones

como la última del señor rajoy son las que han empobrecido las condiciones de trabajo de las y los trabajadores y las que han hecho

mucho menos y que por lo tanto el sistema pase por apuros y además

por la que las pensiones ahora pueden crecer por debajo del ipc y por eso nosotros introducimos estas cosas también

en nuestra enmienda todo esto que ha pasado estos años todas estas modificaciones legislativas que ha habido y que atacan al sistema público de pensiones se han hecho previa campaña de agitación y propaganda para meter miedo a la gente

que en el futuro no iba a haber pensiones y que el sistema no era sostenible y han tenido un efecto

que han querido y muchos jóvenes hoy dicen la frase de que bueno yo mañana no voy a tener pensiones yo no voy a llegar mi grupo

que sí vamos a tener pensiones y que sí vamos a tener unas pensiones públicas dignas porque las vamos a pelear y desde luego hay que pelearlas

pero es verdad que el sistema pasa por un mal momento nosotros creemos que a corto plazo las soluciones pasan en primer lugar

y por evitar por impedir por ley que el gobierno pueda disponer del fondo de reserva como lo está haciendo ahora para otras cuestiones para las que no fue creado y a medio plazo pasa

con condiciones dignas y con cotizaciones altas y eso pasa por derogar las dos reformas laborales de manera especial la del partido popular nuestro grupo nuestra coalición los tres partidos de nuestra coalición desde luego trabajamos en esa dirección y estamos trabajando en el congreso

estamos trabajando en este sentido y por eso incluíamos en nuestra enmienda que este parlamento instase al gobierno

a ir en esa dirección el segundo objetivo que se me va el tiempo era como decía el que está más relacionado con la moción inicial el hecho de que con nuestras competencias nosotros aquí podemos también hacer algo por esas pensiones más bajas que cobran nuestras y nuestros

que ya se está utilizando para eso que es la renta de garantía

las pensiones se dieron aquí algunas de las cifras las pensiones más bajas las que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional en el conjunto del estado

son el treinta y cinco por ciento que es una cifra que a mí no me parece ninguna tontería

el treinta y cinco por ciento la mayoría mujeres porque las mujeres están sufriendo las consecuencias también de un sistema patriarcal

tienen pensiones más bajas porque no trabajaban en el sistema productivo

y las pensiones que están por debajo de los mil euros en el conjunto del estado me parece que alcanzan el setenta por ciento pero aquí también

de las pensiones y por eso con esas cifras nosotros pensamos que sí nos corresponde actuar y porque además tenemos autonomía para hacerlo

a utilizar nuestro estatuto y nuestras competencias para actuar en esta dirección y completarlas y como hablábamos de la rgi nosotros creíamos que teníamos que ser coherentes

plantear que se elimine la disposición famosa de los presupuestos eliminar el siete por ciento que es un recorte nosotros décimos que es un recorte y además nos parece que es una contradicción del gobierno porque se le está lanzando a la sociedad continuamente un mensaje de que euskadi ya está saliendo de la crisis

un recorte del siete por ciento a nosotros nos parece que esta es una contradicción que hay que superar y eliminar ya eso y luego por supuesto volvemos a insistir

la famosa subida del ocho por ciento de la rgi en base

y vamos a seguir insistiendo en esto porque nos parece que lo que no vale es cambiar las reglas de juego a mitad del partido

por el que se subía esta prestación era en base

por qué se cambia justo cuando ese salario mínimo por una vez porque no es lo habitual por una vez subía más de lo normal y subía al ocho por ciento y entonces vamos a aprovechar

y lo hacemos ahora y para mí no es tanto el debate de cuál es el índice al que debamos agarrarnos sino que justo se cambia cuando había subido un ocho por ciento

sobre los pensionistas eso es lo que nos preocupa y por eso pensamos que tenemos que

en la enmienda estas son las razones que nosotros tenemos para hacer esa enmienda yo sé que va a ser

pero nosotros pensamos que con las medidas que incluimos en nuestra enmienda

inste al gobierno mejoraríamos la calidad de la vida sobre todo de aquellos mayores que más lo necesitan porque además como muy bien me ha parecido leer en la justificación de la señora pinedo estas personas no solo sostienen su vida sino que en muchos casos por la situación actual sostienen la vida de hijos

muchas gracias señora presidenta nosotros habíamos entendido que el debate

la renta de garantía de ingresos y sobre la ley de garantía de ingresos y que el debate de las pensiones era otro pero supongo que todo el mundo juega hacer un poco de demagogia con el tema y hoy solo toca hablar de los pensionistas que tienen rentas bajas y no de otros que tienen rentas bajas y están en las mismas circunstancias que los pensionistas o sea que supongo que este debate

hoy va por ahí nosotros habíamos hecho la enmienda que hemos hecho y que es algo que como grupo hemos planteado hace mucho tiempo que la renta de garantía de ingresos hay que modificarla y una de esas modificaciones separar grupos los que están en el mercado laboral de los que no están en el mercado laboral nosotros esto lo venimos planteando hace mucho tiempo porque evidentemente lanbide tiene que actuar de diferente forma con unos que con otros pero bueno ya veo que ese no es el debate

haremos el debate que nos han planteado

hay que complementar las pensiones usted sabe y su propuesta además más o menos lo sondeaba bastante que nosotros en materia de pensiones no tenemos competencia

de regulación de pensiones no está ni previsto sí tenemos competencia en materia de bienestar social y de inclusión social sean pensionistas o no sean pensionistas y eso es lo que nosotros establecimos en la ley que regula la renta de garantía de ingresos

esté porque además de pensionistas contributivos o no

que está incapacitada legalmente no va a poder trabajar

y por lo tanto la renta de garantía complementa a todo eso pero no sé porque se circunscriben ustedes hoy aquí a los pensionistas

clara o evidente a señora pinedo lo que le extrañaba era que había

que o no saben que tienen derecho a eso o las condiciones son muy rígidas las condiciones son las mismas para toda

repito tenemos una ley que establece las condiciones para todo el mundo sean pensionistas o no sean pensionistas y es a lo que se acoge ahora todo el mundo

hernández de podemos nos ha dicho usted que ha salido aquí a convencernos del disparate que usted nos ha presentado porque su enmienda es un disparate no hay por donde cogerlo

cuando el partido popular llegó al gobierno de españa por primera vez el sistema de pensiones estaba quebrado tan quebrado como que hubo que pedir un prestamo para pagar

cuando las cosas fueron mejorando ese gobierno creó el fondo de reserva para que no volviera a ocurrir lo mismo y que cuando haya vacas flacas

para que los pensionistas no pierdan su poder adquisitivo y ustedes nos dicen que se prohíbe

en situaciones de déficit de cotizaciones es que lo voy a leer literalmente

de financiación directas desde los presupuestos generales a mí solo se me ocurre

porque cuando algunos juegan con estas cosas que nosotros tenemos un sistema peculiar de financiación y cuando hablamos que los impuestos tienen que

determinadas competencias o complementos tenemos una competencia exclusiva vía concierto económico y esto puede quedar muy bien sobre el papel

nos puede crear algunos problemas de financiación y me voy a explicar porque cuando se nos dice pedimos la transferencia claro nosotros tenemos un déficit al año

dos mil millónes de euros que viene a ser casi el veinte por ciento del presupuesto anual del gobierno vasco

sin contar los gastos de gestión de esos ingresos y pagos que vienen a ser unos doscientos millónes de euros al año

desde algunos grupos y veo que el gobierno nos ha presentado una enmienda pidiendo la transferencia del régimen yo ya me voy a limitar a leerles cada vez que salga este tema cual es nuestra postura nuestra postura

la enmienda de transacción que presentamos hace un año aquí con el partido socialista el tres de marzo de dos mil dieciséis que decía literalmente el parlamento vasco reitera su defensa de un sistema de pensiones público que garantice la dignidad de las personas al finalizar su vida laboral y cuyo mantenimiento se actualice mediante consenso social y político en el seno del pacto de toledo

respetando el principio de solidaridad y el carácter unitario de su caja tal y como tiene interpretado el tribunal constitucional esto al pnv no le gustaba porque

no es como viene en el estatuto no es como a instancias del gobierno vasco en su día que fue el que recurrió al tribunal constitucional

reiterar la misma enmienda cada vez que salga un tema parecido o similar nosotros cierta coherencia tenemos y señor hernández ataque ideológico el sistema público de pensiones yo entiendo que ustedes acaben de llegar

que haya planteado ningún ataque ideológico al sistema público de pensiones sino todo lo contrario conozco que todos los grupos han trabajado o han intentado mantenerlo y mejorarlo mantenerlo y mejorarlo yo sé que ustedes quizás lo que les gustaría es que se hubiera ido todo al garete para decir que lo van a arreglar quitándoles a los ricos para pagar a los pobres y esas cosas pues lo puedo entender o que usted nos diga

la realidad es que han crecido por encima del ipc esa es la realidad en los dos últimos años que han crecido por encima del ipc

ya sé que también le molesta esto pero eso es lo que ha ocurrido estos dos años pasados el régimen está mal bueno está mal claro que está mal hemos tenido una crisis seis millónes de parados a usted no le gustan las reformas laborales porque usted estaría encantado con que en vez de seis hubiera dieciséis

todas las reformas que han evitado que en vez de seis estemos en tres y vayamos bajando a usted le parecen mal usted prefería que fueran seis siete ocho diez dieciséis

pues yo lo siento mucho las cosas van mejorando y nosotros sí tenemos claro que lo que hay que favorecer es la creación de puestos de trabajo

pueda cotizar y la gente tener las pensiones que le correspondan en base a la cotización

no nos molesta nos parece bien

pero eso no significa que nosotros planteemos que hay que cargarse el sistema público

hemos hecho para mantenerlo desde el gobierno de españa por cierto

hoy están garantizadas porque están como están y porque están donde están y cuando algunos nos dicen desde este lado queremos la gestión

no sé dónde está la mejora posible no se me ocurre pero sí sé que cada vez que se ha hecho la transferencia de la gestión de algún servicio

porque aquí somos los que más gastamos en todo en todo y claro para gestionar un déficit oiga me faltan al año dos mil millónes de euros no sé en qué van a mejorar ustedes la gestión verdad

de incrementar las obligaciones de las cotizaciones de las empresas y de los trabajadores y por lo tanto aunque tuviéramos esa como he dicho yo esa capacidad de recibir esa transferencia tal y como está interpretado ya por el constitucional resulta que a lo mejor tampoco nos interesaba tenerla

brillante negociación con las políticas activas para gastarnos más dinero del que nos estamos gastando ahora pues mejor lo dejamos como está

la renta de garantía de ingresos si hace falta a los colectivos

muchas gracias presidenta para los socialistas una preocupación constante es que las personas puedan vivir con dignidad cuando se jubilan o cuando

por causas inesperadas defendemos el sistema público de pensiones porque es el único que garantiza que todas las personas independientemente de su condición social tengan acceso a una pensión digna hoy la realidad generada por la crisis económica es que el sistema público de pensiones se encuentra

por lo que es urgente arbitrar las medidas necesarias para garantizar el sistema público en condiciones dignas y suficientes la experiencia histórica nos dice que cualquier circunstancia de crisis va a ser aprovechada para que a quienes se resisten a admitir el sistema

la derecha o determinados grupos financieros trabajen para reducir y dar oportunidades a los sistemas privados consideramos que a pesar de las dificultades

intergeneracional y territorial un sistema de reparto soportado en la redistribución de conjunto de recursos generales obtenidos en cada momento

para que cobren pensiones los actuales pensionistas y ellos lo cobrarán con lo que coticen otros así lo puso de manifiesto la consejera de trabajo y justicia

el gobierno del pp ha impedido desarrollar el pacto de toledo y además se han recortado derechos prestaciones y el poder adquisitivo del que disponían pensionistas y jubilados estos sectores apuestan por los sistemas alternativos basados en las aportaciones a planes privados

y este es un sistema que deja fuera a los más desfavorecidos

para los ricos en el sistema público se observa en este momento un desfase entre el gasto que supone el pago de las prestaciones y el ingreso obtenido a través de las cotizaciones

por efecto de la crisis económica en el empleo por su drástica reducción y por consiguiente la reducción de las cotizaciones por la precarización

y los contratos a tiempo parcial que aportan menos desde el punto de vista contributivo por la devaluación de los salarios los trabajadores que inician su vida laboral

insertando en el mercado laboral pero estos además están viendo cómo sus salarios

por el debilitamiento de la negociación colectiva y por otro lado los ratios de trabajadores activos y pasivos se reducen

natalidad baja y la esperanza de vida aumenta el resultado los ingresos

que los gastos menos personas trabajando quienes trabajan lo hacen en condiciones más precarias con sueldos más bajos frente a unos pensionistas que parten de haber disfrutado mejores condiciones salariales y por tanto

por otra parte el fondo de reserva de la seguridad social creado a iniciativa del pacto de toledo y que se incrementó de manera importante en años de gobiernos socialistas hasta alcanzar la cifra de sesenta y seis mil seiscientos dieciocho millónes de euros en el dos mil once ha venido

pero la política de los gobiernos del pp saltándose las propias normas de gestión del fondo los está consumiendo y con las reservas que quedan en el dos mil diecisiete

para dar la vuelta a esta situación y superar este desajuste hay que asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones

y para los socialistas esto pasa por una visión progresista social

y de igualdad efectiva es importante incrementar ingresos a mayores salarios mayores cotizaciones mayores ingresos en definitiva

habrá que combinar este incremento de ingresos por cotizaciones con la participación en presupuestos generales en la financiación de las pensiones incrementando el fondo de reserva de las pensiones es cuestión de cómo se concibe el estado estamos hablando de uno de los pilares del estado de bienestar y estaremos de acuerdo en que su viabilidad se basa en la redistribución de la riqueza generada en nuestro país todo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno de rajoy

poco empleo mal pagado por efecto de una reforma laboral que ha precarizado el mercado de trabajo y hundido la negociación colectiva y para conseguir aumentar los ingresos es necesario

reduciendo empleos temporales y a tiempo parcial así como incrementar los salarios la lucha contra el fraude en las contrataciones también es una medida que debe

parcial recientemente anunciada por la consejera de trabajo y justicia

de pensiones el único que puede garantizar unas condiciones

y superar el riesgo de pobreza que puede ceñirse sobre los pensionistas defendemos el mantenimiento de la caja única de la seguridad social

para todos los trabajadores en españa vascos incluidos es la garantía de pervivencia del sistema de pensiones público sostenible y solidario

sin renunciar a mejorar nuestro autogobierno en esta materia pero también sin poner en riesgo los derechos adquiridos por nuestros actuales y futuros pensionistas

de la seguridad social dentro de un carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad todo ello mediante un convenio tal y como establece la disposición transitoria quinta del estatuto

hay otros informes como el realizado por el secretario de estado de la seguridad social

dos mil quince donde se pone de manifiesto que el déficit de euskadi entre unas y otras se elevaría

e incluso aumentaría con el paso de los años euskadi es una comunidad que no está en situación de donantes sino receptora

de hecho desde el dos mil seis la comunidad autónoma vasca siempre ha estado en números rojos porque nosotros tenemos pensiones más elevadas porque en nuestra comunidad existían salarios más altos estamos de acuerdo con la propuesta de iniciativa de la señora pinedo que nuestra

que les permitan satisfacer sus necesidades vitales

para eso tenemos establecido el sistema a través de la renta de garantía de ingresos para completar las pensiones cuando estas no alcancen

y es una realidad que el gobierno vasco viene realizando un gran esfuerzo en el complemento de las pensiones bajas a través de la renta de garantía de ingresos el objetivo

la viabilidad del sistema para toda una generación creemos en el sistema y no podemos ni debemos dejar a nadie atrás pero

se trae al pleno ha de ser tratada en lo que tiene que ser la reforma de la garantía de ingresos

en todo su conjunto en el parlamento y no de una forma aislada creo más que nunca

sistema fundamental para la cohesión y la justicia social pero hagámoslo donde hay que hacerlo y en su conjunto dentro de la reforma

que pronto abordaremos por eso defiendo la enmienda a la totalidad

al acuerdo que llegamos entre nacionalistas vascos y socialistas vascos donde se instaba al gobierno del estado incumplimiento del estatuto de autonomía de gernika transfiera en la mayor brevedad la gestión del régimen económico

a euskadi hoy no hemos conseguido ningún tipo de acuerdo cada uno de los grupos hemos defendido nuestra postura estamos

a los problemas existentes en la actualidad en el sistema público de pensiones tenemos un complemento a través de la renta de garantía de ingresos

ahí todo en su conjunto y no aprobando parches separados de ella
eso es lo más lógico y coherente a futuro nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea

compartimos que de cara al objetivo de construir una sociedad avanzada y justa tiene una extraordinaria importancia dotarnos de un sistema de protección potente coherente

y ahí tenemos las leyes de protección social de dos mil ocho avanzadas y extremadamente ambiciosas por utilizar las palabras empleadas por el ararteko la semana pasada también al igual que su grupo entendemos el sistema de pensiones como un pilar fundamental

y es una preocupación y ocupación constante del gobierno vasco el dotar de dignidad a las personas a través de las políticas públicas estamos convencidos y convencidas que los seres humanos merecen un trato especial y digno que posibilite su desarrollo

que nos ocupa son merecedoras como grupo especialmente vulnerable en muchísimos casos de una especial protección para salvaguardar su dignidad y por ello

la transferencia de la gestión de las políticas pasivas de empleo y del régimen económico de la seguridad social

es necesario disponer de todos los instrumentos económicos

para conectar de manera más eficaz las políticas pasivas y prestaciones de desempleo con las acciones formativas y de inserción que ya ejerce lanbide en las políticas activas a este respecto y de conformidad con el artículo dieciocho punto dos la disposición transitoria quinta del estatuto de gernika plantearemos al estado como prioritaria

en el seno de la comisión mixta de transferencias de los correspondientes que regulen la citada transferencia desde el respeto al principio de solidaridad y al carácter unitario del sistema más allá de las interpretaciones que al respecto hace

y porque ha quedado suficientemente demostrado y acreditado que cuando las transferencias de competencias han sido asumidas por el gobierno vasco la gestión de las mismas

mejor por ello porque es de justicia y plenamente respetuoso con la legalidad vigente exigimos la gestión del régimen económico de la seguridad social porque ya sé señora pinedo lo que me va a decir en la réplica que usted hablaba

que lo que tenemos que hacer es ir al fondo del asunto y por eso y exigimos la transferencia de esta competencia estamos seguros que con dicha gestión realizada directamente por el gobierno vasco podremos dar una mejor

por lo tanto para finalizar las situaciones de escasos recursos que puedan tener algunas personas algunas pensiones en los ciudadanos y ciudadanas vascas están siendo atendidas de forma adecuada por parte de la renta de garantía de ingresos como bien saben el gobierno

elaborando un informe que servirá de base para afrontar una posible modificación de la normativa reguladora de estas prestaciones y ayudas por lo que estoy segura tendremos tiempo de continuar profundizando en esta cuestión y creo que hacerlo aquí jueves tras jueves podría resultar un parcheo mientras que cuando tenemos ahí

en su globalidad que va a ser presentado en este parlamento y que tendremos tiempo de debatirlo a fondo y para finalizar no tengo la menor duda

a la vez que continuaremos reivindicando la transferencia de la gestión económica de la seguridad social hasta conseguirlo mila esker eskerrik asko arregi andrea

bai eskerrik asko voy a leer moción sobre las medidas que va a adoptar el gobierno vasco

de la comunidad autónoma vasca este era el título de la moción

compra otro y ya está señora sánchez

un minuto de ese reloj es el que ha dedicado usted a hablar en

del complemento de pensiones en los diez minutos que ha tenido un escaso minuto

el debate ya se dará cuando tratemos la reforma de la ley acaso en mi moción decía que no ya se la ha leído

en esa nueva reforma en la reforma de la ley de la rgi en ningún momento

mínimos unos mínimos sobre qué dirección iba a tomar

ni cuánto tenía que ser el complemento de pensiones

ni nada parecido un minuto de diez eso sí nos ha explicado todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social en relación al estado y la postura del partido socialista tres cuartos de lo mismo el señor damborenea

según él acuciado por el resto de intervenciones por lo tanto

no voy a decirle mucho más pero sinceramente la propuesta del partido popular en relación a la rgi nosotros no podemos esperar nada menos malo nada menos malo

y la postura que el partido popular defiende en relación a la renta de garantía de ingresos que ya sabemos todos y

que no tenemos competencia claro ya lo he dicho por eso he dicho con las competencias que hoy tenemos con las herramientas que hoy tenemos podemos y debemos hacer todo lo posible para que no haya ni un solo pensionista en la comunidad autónoma que no pueda llevar unas condiciones de vida dignas porque su pensión no se lo permite ha sido mi frase con lo que tenemos ahora podemos hacerlo y no estar esperando a esa transferencia que usted ha dicho

por el desagüe con un déficit que le recuerdo todas las comunidades autónomas actualmente tienen déficit también la señora sánchez ha entrado por el mismo y nos han vuelto a hablar de la caja única

hablan en el gobierno porque no tiene nada que ver con lo que ustedes y nosotros firmamos la anterior legislatura en relación a la transferencia de la seguridad social

que no son ni las que el señor damborenea ha defendido y siento decirle que no son

este gobierno y yo otra vez me circunscribo a la moción y a la finalidad de esta moción quieren o no porque claro

la ley a debate van a apoyar que haya más pensionistas que puedan tener derecho a este complemento de pensiones sí o no van a apoyar

pueda ser un poquito más digna si quiera sí o no porque ese es al final del debate van a hacer ustedes algo por dignificar las pensiones o por lo menos

en camino de que las pensiones que reciben los pensionistas en nuestro país sean más dignas o se van a quedar en el discurso fácil de que el gobierno sigan haciendo que es a lo que nos tienen acostumbrados a que el gobierno siga haciendo

porque lo siento hay más de quince mil novecientos personas en este país con pensiones que no son dignas

hay muchos pensionistas que lo están pasando mal y no pueden acceder por diferentes razones y señor damborenea sí hay pensionistas que no saben que existe eso se lo digo yo porque he tratado con muchos de ellos y he sido yo la que les ha informado de que tenían este derecho en muchas ocasiones vida fuera de este parlamento en mi trabajo anterior eso es así entonces que hay que ir al asunto que el asunto es el tema de la transferencia

que no que no que hoy el debate no era ese que hoy el debate era

que mal pinta viendo los compañeros de viaje que se está buscando el partido nacionalista vasco en estos menesteres y en otros menesteres porque de verdad

nada bueno como diría aquel que yo me sé teniendo en cuenta el apoyo del partido popular

qué dirección puede tomar esa nueva reforma eta bukatzeko benetan pentsionistak hor kanpoan daude

desviar el debate y yo creo

de la cuestión concreta pero yo cuando miro una moción sí es verdad que atiendo al debate

de sistema de pensiones y a nosotros nos parecía importante hablarlo

en su globalidad y por eso he planteado yo en los términos que he planteado antes

pero si el problema es que hay que completar a pensionistas de nuestras comunidad porque cobran pensiones bajas con lo cual nosotros estamos de acuerdo ya décimos que apoyábamos la moción hay que hablar de por qué

al sistema público de pensiones y de ahí el discurso que yo he hecho antes y algunas cosas que se han dicho o al menos una en concreto del señor damborenea hay que decir por lo menos que es mentira yo creo que no se debe

pero usted ha dicho que no había aquí ninguna propuesta clara concreta lo ha dicho usted

porque hay al menos una propuesta clara y concreta que es aumentar ese complemento de las pensiones a través de la rgi y además subir el tope

a usted no lo sé pero es una propuesta concreta no diga que no la hay usted habla de que nuestra enmienda es un disparate bien es lógico que

le parezca que es un disparate pero solo alude a una sola cuestión para calificarla como disparate

del fondo de reserva nosotros vamos a insistir en que esto no solo es un disparate sino que lo defendemos

las carencias del sistema con un fondo de reserva que no debería ser utilizado para eso entre otras cosas porque es de las y los trabajadores no del gobierno de turno que tiene que ir tapando los parches que tiene el sistema y por eso lo décimos y creemos que no es un disparate

es que usted hable de que efectivamente la mejora del sistema pasa por mejores cotizaciones por mejor empleo etcétera estamos de acuerdo y a la vez hayan hecho ustedes una reforma laboral

un empobrecimiento de los salarios y de las cotizaciones en general nosotros pensábamos

que lo que se proponía aquí o las dos cosas que nosotros proponíamos aquí eran importantes lo que podemos hacer aquí

si luego se va a hacer en el debate de la rgi por nosotros estupendo aunque pensamos que para alguna de las cosas que hemos planteado ya viene tarde

de la adicional y la subida del ocho por ciento me imagino que cuando debatamos ese tema aquello

este tema y bueno a nosotros nos preocupa esta cuestión ya lo he dicho antes no me voy a reiterar porque conocen ustedes nuestra posición

que se hable de que esa subida no puede ser porque eso desincentiva a las trabajadoras y trabajadores a buscar trabajo a nuestro grupo esa declaración nos parece especialmente grave lo digo de verdad porque nos sitúa a quienes nos consideramos trabajadores

y eso es muy peligroso yo le pido al gobierno que no use ese discurso porque es el discurso clásico de la derecha más rancia

y a mí me gustaría que ustedes no estén en esas posiciones hoy no va a salir nada de aquí nosotros

este debate en los dos términos porque pensábamos que eran necesarios y complementarios y porque nos parecía que el debate no tenía que ser además hoy ese sí que no tenía que ser hoy tanto

la transferencia el de si lo vamos a hacer mejor cuando tengamos esas competencias o no porque para nosotros lo importante era constatar que había una iniciativa

hay muchísimas la mayoría de las pensiones que son insuficientes para una vida digna y qué podemos hacer nosotros para mejorarlo y nosotros pensábamos que eran estas dos cosas por un lado instar al gobierno del estado para ir en esa dirección que nosotros decíamos

las pensiones aunque otros grupos no estén de acuerdo yo entiendo que el partido popular no esté de acuerdo con nosotros me parece lo natural

que era la de mejorar los complementos que tenemos qué podemos hacer nosotros desde esta cámara dos cosas que nos parecían importantes y que es lo que hemos planteado eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señora sánchez partido socialista el gobierno del pp

que fue del partido socialista solo

partido socialista y le voy a recordar que ese mismo gobierno

y una de ellas era que el fondo de reserva se invirtiera en bolsa porque como la bolsa crecía mucho

se nos pusieron los pelos como escarpia y eso conseguimos pararlo en el congreso de los diputados porque si no no

nada del fondo de reserva y por lo tanto

pues si no hubiéramos cambiado el modelo que ahora tanto le disgusta hace dos años pues los pensionistas tendrían que haber visto reducidas su pensión porque si el ipc baja y la pensión tiene que ir conforme al ipc pues habría que haberles rebajado la pensión y no lo hemos hecho

el partido popular no ha bajado las pensiones las ha subido pese a que la inflación era negativa en el quince y en el catorce siento que les moleste a ustedes tanto no poder decir lo contrario pero como no queríamos bajarlas pues modificamos el sistema para que siempre suban y que no pueda venir un gobierno a congelarlas como pasó

al partido nacionalista vasco más allá de lo que interprete el tribunal constitucional

cuando hay discrepancias sobre cómo se interpreta algo pues se acude a los tribunales que resuelven esas discrepancias y aquí los que

también socio del partido nacionalista vasco y el gobierno vasco recurrió y el tribunal constitucional dijo así y a ustedes no les gusta

ustedes siempre mejoran si nos pasó con las políticas activas fuimos la última comunidad en recibirlas diez años sin recibirlas todas las demás las tenían

con el señor lópez y con el partido socialista que la primera prioridad del nuevo gobierno de aquel era hacer esa transferencia y se metieron ustedes por medio

y consiguieron que tuviéramos también la bonificación de los contratos cincuenta millónes de euros al año nos ha costado esa gran gestión desde entonces

y anda que no lo avisamos que el que estaba encantado era el ministro de hacienda

la señora pinedo nos dice que en materia de renta de garantía de ingresos del partido popular solo se puede

algo malo o lo peor curiosamente usted y estos señores y aquellos señores se han pasado los últimos cuatro años defendiendo la ley

con el partido socialista no se ha podido tocar en la legislatura pasada ni una coma porque no había que tocar nada cuando nosotros lo proponíamos ahora parece que todo el mundo está un poco de acuerdo en que parece que algunas cosas hay que retocar

pero hombre tan mala no será la ley del partido popular cuando ustedes llevan ya seis años y se han negado a tocar ninguna coma todos ustedes por lo tanto en fin un poquito de coherencia

se lo he dicho antes pero por qué plantea usted que hay que subir solo a los pensionistas hay mucha más gente que los pensionista con pensiones bajas que tienen derecho a cobrar la renta de garantía de ingresos y además no están en el mercado laboral se lo he dicho por qué plantea solo eso usted me dice que hay más de quince mil novecientos que tienen pensiones bajas pues sí es posible si yo no se lo voy a discutir

pensiones bajas pero además tiene otros ingresos y cuando nosotros y todos planteamos

lo planteábamos en función de los ingresos totales

no de un ingreso parcial sea de la pensión o no

claro vamos a ver esto de coger el parámetro de las pensiones bajas no no el parámetro son los ingresos

que el debate no era de pensiones es de ingresos que además es donde tenemos competencia a podemos me dice

ni clara ni concreta para financiar ese gasto y el disparate

no era solo que no se use el fondo que es para lo que se creó para mí también es un disparate que ustedes nos planteen que hay que subir un quince por ciento la renta de garantía se lo digo así de claro cuando a los pensionistas no se les va subir eso a los funcionarios no se les va a subir eso

que la renta de garantía de ingresos hay que subirla un quince por ciento eso también nos parece un disparate

si se gana lo mismo o si se cobra lo mismo trabajando que sin trabajar

no desincentiva yo le voy a recordar esos paraísos que a veces nos ponen ustedes de referencia esos paraísos en los que todos ganaban lo mismo y al final nadie trabajaba

si está de acuerdo en el debate de que efectivamente tenemos que abordar en conjunto toda la reforma de la

parciales que afectan directamente sobre el contenido o parte del contenido de todo lo que pueda afectar a esta reforma que próximamente vamos

realizar parches usted hacía referencia el otro día a los parches pues yo se lo recuerdo no podemos hacer reformas de parches porque luego vamos a incidir en ese conjunto que queremos estudiar globalmente para ver todo lo que se pueda mejorar para perceptores de rgi

y para todos los demás los dos aspectos del debate son importantes usted solo se quiere ceñir en que usted quería

a todo lo que planteaban con respecto a los complementos de pensiones pero no es exactamente así primero porque tenemos un debate próximamente

porque la situación que hay ahora mismo a corto y largo plazo como he dicho

de pensiones tiene una gran importancia y se están dando una serie de cuestiones que están incidiendo

que a futuro pueden tener una gran importancia y unas consecuencias negativas para todos los ciudadanos señor

también es mejorar las pensiones y mejorar su cuantía mejorar el incremento de las cotizaciones a través de un incremento en los salarios que es todo lo contrario a la situación que ahora mismo estamos viviendo después de la reforma

menos pensión porque ustedes dicen que no han bajado las pensiones pero han hecho una reforma de las pensiones donde los pensionistas empiezan a perder poder adquisitivo de una forma muy importante y usted dice no se han bajado no pero pierdo poder

para nada para lo mismo el dinero que cobran a lo que les llegaba hace

empeorando a medida que vayan pasando los años y por otro lado dicen gracias a dios que nosotros entramos ahí

qué me están contando decir que gracias a que nosotros hicimos nosotros dejamos un fondo de pensiones con mucho dinero y ustedes en el tiempo que llevan lo van a dejar a cero este año o sea no me venga encima diciendo que qué buenos somos que qué bien lo hacemos porque los que han conseguido acabar con el dinero que existe en ese fondo de pensiones son ustedes

para que eso se corrija porque eso sí que va a tener una gran incidencia en un futuro porque el fondo de pensiones sirve de colchón para poder seguir

a situaciones como la que estamos teniendo y ustedes nos lo están dejando a cero con lo cual

importante problema nosotros por tanto mantenemos nuestro compromiso solidario con el resto de trabajadores y pensionistas en españa y mejorar nuestro autogobierno en esta materia en aquello que no rompe el principio de solidaridad trabajando por la gestión del régimen económico de la seguridad social sin poner en riesgo los derechos adquiridos por nuestros actuales pensionistas

digna complementada a través de las redes sociales que atiendan todas las necesidades de nuestros mayores vivan en la localidad

convencida de que aunque hoy no hemos llegado a ningún acuerdo en esta materia

vamos a poder tener oportunidad para poder llegar a acuerdos en un futuro y espero que exista unanimidad cuando tengamos que debatir esa reforma de la renta de garantía de ingresos que también afecta al tema

al partido popular y a bildu decirles decía la señora pinedo que la moción de hoy era

concreta que se trataba y lo que pedían era completar las pensiones

pero usted tiene la suficiente experiencia parlamentaria y el señor damborenea

al respecto cuando usted le formuló la interpelación por dónde

iba a ir por lo menos el debate en cuanto a los grupos que apoyan el gobierno porque evidentemente la respuesta que se le dio fue relacionada con la transferencia de la gestión del régimen económico de la seguridad social y como usted comprenderá

mantienen la misma línea de defensa

que es previo creemos que de esta forma se atajaría de raíz el problema y no vía parches como le han dicho algunas de las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra creemos que en este momento que se está tratando de forma

general y conjunta una posible reforma de la rgi creemos que el decir ahora vamos a incrementar en décimo o en y a los pensionistas

un parcheo y mañana podríamos venir con una iniciativa para incrementarla a otro colectivo

respecto al tema del déficit del sistema público que se hablaba hombre decir que en euskadi es deficitario y que por eso es mucho mejor que no tengamos la transferencia creo que a día de hoy no tiene ningún sentido y que ese argumento cae por su propio peso

es deficitario en todas las comunidades autónomas y además en euskadi durante muchos años no lo ha sido por lo tanto creo que ese argumento cae por su propio peso

en cuanto a la postura del representante de podemos

decirle que ha explicado muy bien cuál era su postura los objetivos que buscaban con su enmienda pero es verdad también que

intervención ha sido dedicado a medidas que han de implementarse en el congreso de los diputados que espero que allí se tenga ese debate y consigan

lo que plantean nosotros también abogamos por un sistema público de pensiones yo creo que en eso estamos todos los grupos de acuerdo y utilizando sus palabras mal relacionado con nuestras competencias y en

usted habla de la eliminación de la disposición que rebajaba en un siete por ciento que se implementó con el gobierno del señor lópez y también hablaba del tema de que se pueda incrementar un ocho por ciento de acuerdo

cambie esa referencia al salario mínimo interprofesional en alguna ocasión ya lo hemos mencionado pero le recuerdo

se anuló se quitó de la normativa de nafarroa con el voto favorable de podemos de euskal herria bildu y de geroa bai y allí no ocurrió absolutamente nada y no se ha montado

como se quiera llamar la discusión que se está generando aquí de todas formas el debate de presupuestos está abierto todavía estamos

bueno ya han anunciado cuál va a ser su postura pero ahí podremos seguir debatiendo

sobre todo esto creo que en el momento que se traiga ese

más que suficiente para tratar el tema de las pensiones y muchos otros más y de los diferentes colectivos pero todo en su conjunto y de forma global creo que lo contrario sería poner parches y estoy de acuerdo con lo que le decía el señor damborenea

de los pensionistas porque puede haber pensionistas que tengan patrimonio y qué pasa que a esos también por el hecho der ser pensionistas y tener una pensión baja

creo que eso no es lo que la iniciativa original buscaba y creo que tenemos que ser y contemplar esta situación en su globalidad besterik ez

eskerrik asko presidente legebiltzarkideok presentamos en el día de hoy esta proposición no de ley

los entes subestatales tanto este legislativo como el propio gobierno en la contribución a la construcción de una sociedad internacional

artean esta misma semana hemos tenido en la comisión de asuntos exteriores

cuentas del proceso de diálogo y del acuerdo de paz

que ha tenido lugar en la habana y que han acordado entre las farc y el gobierno de colombia con la mediación de los gobiernos de cuba noruega y

y de venezuela en dichas negociaciones

reforma rural integral participación política fin del conflicto solución a los cultivos ilícitos el tema de las víctimas y la propia implementación y verificación

someramente pasaré a comentar que la reforma rural es vital ya que es la fuente primigenia del conflicto el reparto de la tierra en colombia y que se va a proceder al reparto de diez millónes de hectáreas entre el campesinado colombiano

a los cultivos ilícitos en los que se apostará por la sustitución de estos cultivos por

aquí la comunidad internacional tiene un papel fundamental que jugar en el combate contra el tráfico de drogas no menos importante o fundamental ha sido la participación de las víctimas del conflicto en las propias negociaciones y en los acuerdos que se han tomado participación en las negociaciones y sobre todo también

a las mismas además se ha acordado un sistema de justicia del que hay mucho que aprender basada en el fomento de la justicia restaurativa en la que se fomenta el esclarecimiento

del daño causado de forma temprana además sabemos

mayor y una de las novedades principales de esta negociación ha sido precisamente esta la participación de las mujeres a través de la subcomisión de género en esta negociación y también

en los propios acuerdos si bien es cierto que lo que se ha aprobado en líneas muy generales es esto es necesario un esfuerzo adicional y de ahí nace también esta

humildemente también desde euskadi a ese proceso

dificultades entre otras es verdad que se han creado unas zonas transitorias en las que la guerrilla se va reagrupando y donde tienen que ir

a una vida normalizada en el conjunto de colombia pero sí que es verdad que el gobierno colombiano no ha cumplido con las condiciones mínimas que exigen estas zonas y no es posible lo que se suele decir que los guerrilleros vuelvan a sus casas tras cincuenta y dos años de guerra en

la tienen tampoco han sido definidos los programas de acceso al empleo proyectos productivos de desarrollo agrario de sustitución de cultivos ilícitos

las armas uno de los temas que más crisis está suscitando es la no implementación de la ley de amnistía

no se propone una amnistía generalizada sino solo y exclusivamente de los delitos de rebelión y conexos a los mismos hay setecientos posibles personas

de esta medida y escasamente han sido setenta las que hasta ahora lo han sido uno de los temas fundamentales en colombia no en este proceso de paz sino en todos han sido las garantías de seguridad y el papel del paramilitarismo

muestra su preocupación acerca de ello una actividad paramilitar que no está siendo suficientemente perseguida por el estado colombiano la fiscalía general de la nación está poniendo trabas a la creación de la unidad de investigación especial que se propone

que sustentan esas estructuras paramilitares

porque hay que recordar que en el año dos mil dieciséis y dos mil diecisiete son más ya de ciento treinta dirigentes políticos sociales de

asesinadas en colombia una de las últimas ya hizo este parlamento una declaración institucional en condena de ese asesinato fue emilsen manyoma mosquera y además cabe recordar que en otros procesos de paz la

de completa impunidad y de asesinato masivo como lo fue por ejemplo con uno de mis fuerzas hermanas en colombia que fue la unión patriótica evidentemente el cumplimiento de lo acordado es una obligación reciproca para los firmantes de cualquier acuerdo

están cumpliendo con el proceso de dejación de armas el gobierno y las instituciones competentes deberían cumplir con los contenidos de seguridad jurídica que les incumben así como la detención de los responsables de los crímenes mencionados contra los defensores del proceso

se preveía un acompañamiento internacional en la implementación de todos los puntos pues bien hasta ahora en este momento la misión internacional solo y únicamente se circunscribe a la dejación de armas por parte

que podemos jugar porque si estas situaciones y así nos lo adelantaban también en la comisión de asuntos exteriores y europeos estos asuntos no se van resolviendo de aquí al uno de junio es verdad que la implementación del proceso de paz corre serio riesgo de continuar

si los acuerdos no se llegan a cumplir y sobre todo a mí

que hemos conseguido acordar entre los grupos parlamentarios de elkarrekin podemos

bildu es el papel que puede jugar euskadi como papel activo

como un actor fundamental en la comunidad internacional

instancias estos pronunciamientos este que va a hacer hoy el parlamento vasco

y el que hizo el parlamento europeo pero son fundamentales también los programas de cooperación internacional son vitales por ejemplo estos programas para las áreas de víctimas de reincorporación de guerrilleros a la vida

la justicia de infraestructuras etcétera etcétera por eso se hace imprescindible el incremento y la creación de programas específicos desde la agencia vasca de cooperación y desde otras instituciones vascas para acompañar este proceso de paz

en colombia y aquí al margen de la unanimidad que tenemos para la proposición no de ley no voy a desaprovechar la ocasión para decir lo que hemos encontrado en el proyecto de presupuestos de este año que es una reducción

de cooperación y además que esto se une a los ya anteriores

no se va a cumplir la ley en esta legislatura y tampoco se va a cumplir la ley vasca de cooperación y tampoco se van a cumplir las líneas y las orientaciones generales que este parlamento dio en el año dos mil catorce para la política de cooperación

porque estamos hablando de una ley una ley con un consenso social enorme como fue la ley vasca de cooperación y un incumplimiento

a todas luces va a hacer este gobierno de esa propia ley además de los programas de cooperación internacional tenemos el programa y el fortalecimiento del programa de defensores y defensoras de derechos humanos como también tenemos y desde organismos colombianos también nos están pidiendo la participación emisión de verificación y observación tanto el parlamento como el gobierno vasco

en colombia así lo traeremos y así lo llevaremos a la propia comisión

original había un punto que nuestro grupo parlamentario lo consideramos fundamental y vamos a traer ese debate aunque

lo hemos eliminado que es el papel y abrir un debate también en euskadi como se ha hecho en otras comunidades autónomas y también esperemos que se abra también en el congreso sobre el rol de las empresas y

de relacionarse con las sociedades en las que se hacen los negocios y también con el cumplimiento de los derechos humanos no estamos señalando a nadie yo eso quiero que quede claro si no que estamos hablando de creación de un debate y de creación de un observatorio como por ejemplo se creó a través de una proposición no de ley aprobada

un observatorio de multinacionales en euskadi llevaremos ese debate adelante y quería explicarlo porque estaba en la proposición original

y felicito y nos felicitamos del acuerdo y también del debate que hemos tenido en estos días con los grupos que hemos firmado la proposición no de ley yo creo que se recogen

de los cuatro grupos acabamos anoche de hacerlo y sobre todo recordar que como siempre

sin justicia sin reparación sin verdad y sobre todo sin justicia social eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

eskerrik asko han sido más de cincuenta años de lucha de lucha por conseguir que tanto anhela el país una paz real no solo el fin del conflicto armado porque ya lo decía rigoberta menchú no puede haber paz

que es cómplice de la explotación infantil que vulnera los derechos sexuales y reproductivos y que utiliza a las mujeres como arma de guerra que nos respeta el medio ambiente

para que arrasen con sus recursos naturales esos recursos que pertenecen única y exclusivamente al pueblo colombiano

no es únicamente ausencia de violencia ausencia de guerra

por ello tenemos que tener la mirada puesta en la implementación

eraldatu hobetu eta hala nahi badute jaioterrira itzultzeko aukera izatea es importante que colombia sepa que desde la comunidad internacional en este caso desde este parlamento y desde nuestro grupo euskal herria bildu

apostando por el diálogo como la única vía para la resolución del conflicto que mostramos nuestro más profundo rechazo a la presencia de las trasnacionales

una colombia soberana por una colombia plural en definitiva por una colombia

señoras y señores parlamentarios votaremos a favor de la enmienda de transacción

mi grupo presentó una enmienda de totalidad en línea con las principales declaraciones de apoyo al proceso de paz de colombia además del propio proceso estrictamente interno de la república de colombia y en ese sentido

claramente recogidas en el texto que hoy vamos a apoyar el apoyo internacional fue solicitado por el proceso fue solicitado por los intervinientes y los firmantes

relevantes que sirven y que siguen sirviendo de guía para el apoyo europeo al proceso colombiano y que siguen presidiendo las posturas comunitaria o la postura

otros ámbitos políticos y las cuestiones que plantea esta proposición no de ley

en esos acuerdos incluso ampliados porque también en esos acuerdos

económicos de fondos de ayuda y de cooperación y de desarrollo y de colaboración con el proceso que saludamos desde luego desde aquí también hay que recordar que el propio ministro de asuntos exteriores del gobierno de españa en su reciente comparecencia indicaba el compromiso de españa con el proceso de colombia y decía en esa comparecencia

el reto esperanzador de contribuir a la construcción de la paz en colombia atendiendo a muchas consideraciones

es unánime en la comunidad internacional en el consejo de seguridad como miembro no permanente españa

política en colombia con determinados miembros asimismo el apoyo del proceso es unánime en el parlamento

privilegiada con el gobierno y con la oposición colombiana lo que nos permite un papel constructivo para tender puentes nuestro apoyo al proceso de paz es cierto y ha de ir acompañado de algo más de palabras

ya viene siendo ese caso hemos dedicado decía el ministro ochenta millónes euros

de seguir contribuyendo dentro del marco de asociación país durante el periodo dos mil quince dos mil diecinueve y se han comprometido a realizar

se contribuye desde el gobierno de españa al fondo fiduciario de la unión europea

que se está avanzando por ahí no les voy a recordar puesto que

de lo que es el acuerdo y las referencias

se produjo en relación con el apoyo al proceso de paz de colombia una declaración institucional general pero concreta

democráticos los instrumentos políticos los instrumentos españoles

recordar la resolución del parlamento europeo

con una serie de pos posturas y de puntos de referencia muy claros

de los derechos humanos en colombia una serie de consideraciones de cómo había discurrido todo ese proceso detallando desde luego los principales hitos del proceso y también las consideraciones finales en relación con el reconocimiento del esfuerzo al gobierno a sus interlocutores

de liberación nacional para comprometerse también

proclamar que la violencia no es el método legítimo de la lucha política

post conflicto o sea que en ese sentido y muchas otras cosas más que decía la iniciativa la resolución que también se aprobó por el parlamento europeo también hemos de recordar que

en el proceso han intervenido en el referéndum de observadores otros eurodiputados como el señor jáuregui también participaban de esa misión

siguen apoyando el proceso y las referencias al proceso

votaremos a favor de la iniciativa eskerrik asko barrio jauna

sí compartimos la preocupación por el acuerdo de paz en colombia

un nuevo pronunciamiento de este parlamento vasco en apoyo de colombia y del pueblo colombiano porque colombia se encuentra viviendo

después de cuatro décadas el dos mil dieciséis fue finalmente el año de la paz

incluido pero la firma de los acuerdos no ha supuesto el fin del proceso de paz hay que tomarlos en serio no se puede pensar que aquí resuelto la firma del acuerdo fue el verdadero comienzo del proceso

porque hay que entender que este proceso no consistía solamente en la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de colombia

mucho más amplio un conflicto histórico y sentar las bases para que no se repita o degenere en otra cosa

es sobre todo una oportunidad para entrar en una verdadera transición hacer lo que no se ha hecho en cincuenta años acabar con todos los resquicios de violencia asegurar que la democracia abarque a todo el territorio como garantía de derechos de todas las colombianas y los colombianos por igual

todos parte de un mismo país y de una misma sociedad los y las socialistas no hemos dudado en desarrollar

y la violencia en colombia y el apoyo también a la política

y el diálogo porque entendemos que el diálogo y el interés por la paz crea posibilidades de verdad de solucionar las cosas

vuelvo a decirlo sigue siendo necesaria no podemos olvidar lo han citado los intervinientes anteriores que la actividad violenta sigue causando dolor a la sociedad

aún no parecen tener un ritmo adecuado ni conseguir el cese de la violencia sino también por la actividad paramilitar una violencia que debo decir se viene cebando en las organizaciones sociales como lo ha dicho con otros datos el proponente es el año dos mil dieciséis

de asesinatos de líderes sociales lo digo además

lugar a dudas de la intencionalidad miembros destacados de movimientos sociales el medio rural

y de indígenas también medioambientales y afro descendientes

a un recrudecimiento del paramilitarismo luego le llamen como le quieran llamar en conclusión que se mantiene la violencia por algunos sectores en colombia y eso también debe tenerse en cuenta a la hora del final

en colombia estamos hablando de un proceso mucho más selectivo esperamos que no estemos hablando de una transformación de la violencia en colombia por eso entendemos que

va a ayudar al pueblo colombiano como lo ha hecho en otras ocasiones también el gobierno y el parlamento vasco con el pueblo de colombia

mencionado dos de los intervinientes anteriores o los tres estamos hablando de la ejecución del desarrollo rural que integra las regiones de colombia de llevar a la realidad el sistema integral de verdad justicia y reparación de todas las víctimas con identificación

las responsabilidades y entrar en una verdadera lógica de paz y convivencia esto es

que si bien no se trata de abrazar al otro sí lo es de demostrar una disposición a convivir con la otra y eso no se ha producido porque como nos decía el señor santiago la proximidad electoral que se van a juntar todos los procesos el próximo año

el desarrollo más ralentizado de los acuerdos de paz y que puede afectar al proceso porque hablamos del incumplimiento de la ley de amnistía o no colaboración con el poder judicial de colombia

de los asesinatos del líderes sociales y de la reincorporación

compartimos de indefinición afecta al futuro inmediato afecta al

sean implementados con la voluntad que antes he mencionado de una resolución integral para hacer una colombia de todos y todas las colombianas

en estos momentos estamos asistiendo a una profunda transformación de la sociedad colombiana

y la justicia postconflicto van a tener una enorme importancia y creo que para ello va a ser clave la implicación del estado en la resolución de los problemas que dieron lugar inicialmente

y después a la creación o nacimiento de muchas guerrillas todas las partes de aquí en adelante

y van a tener derecho a la reparación pero todas las partes también se van a tener que implicar formalmente y con garantías reales en el desarme y en el cese de las acciones que durante cincuenta años han traído tanto sufrimiento en colombia y en otro ámbito también se ha citado aquí

del ejército de liberación nacional y de los paramilitares

han tenido consecuencias sobre la población rural campesina que no solamente ha sido desplazada sino que también ha sido sometida a violaciones de derechos humanos porque como decía

como no desaparezca el negocio de la droga en colombia no va a haber una paz

otro aspecto que a mí me parece relevante en la resolución del conflicto va a ser el empoderamiento de las mujeres no solamente la participación de las mujeres

y no solamente porque las mujeres componían el cuarenta por ciento de las guerrillas

en colombia que es una sociedad especialmente machista y va el respeto escrupuloso por todas las partes de los derechos humanos fortalecer el estado de derecho y asegurar los derechos fundamentales de todas las personas va a ser va a tener que ser el compromiso de este gobierno y de los demás que lleguen

de este año yo como europeísta convencido pero también crítico cuando europa no funciona o cuando los estados miembros de la unión

quisiera sin embargo subrayar aquí el papel clave

ha sido una implicación exitosa sobre todo por parte de la comisión y el apoyo

al proceso colombiano o el apoyo al proceso de paz colombiano ha sido desde el primer momento ha habido todo tipo de gestos como la firma del acuerdo comercial unión europea colombia trato de libre comercio que por cierto en esta cámara

pero también otras medidas financieras de ayuda de envío de delegados especiales de la comisión europea y yo creo que esto demuestra que la unión si quiere

de cuál es su papel en el concierto de las naciones pues puede jugar un rol importante

en el mundo internacional pero hablando de una sola voz y con ideas claras y creo que aquí el papel de otra mujer federica mogherini

la política de seguridad ha sido clave beraz espero dugu

a todos señoras consejeras hoy planteamos un debate que no es nuevo en esta cámara hemos tenido oportunidad de debatirlo en la legislatura pasada entre otras es un debate que además planea permanente sobre los debates de educación y es un debate además que entendemos

coincidencia generalizada al menos cuando nos manifestamos sobre esta materia de una manera digamos política o genérica quién va a ser el que se oponga formalmente a que nuestros chavales y chavalas aprendan inglés

verdad el problema es cuando luego hay que pasar a los hechos y a lo concreto hay que implementar las políticas necesarias para que esto sea una realidad para que euskadi en definitiva se asemeje y se equipare no solo al resto de españa al resto de comunidad autónomas que están por encima de nosotros

espejo en el que nos miramos muchas veces sobre todo cuando se buscan referencias en materia educativa es un debate importante y fundamental porque estamos hablando de la parte de la sociedad

o sobre la que también debemos de poner nuestras prioridades no solo hablamos de los jóvenes como elementos del presente sino que también coincidimos todos

el país del futuro quienes van a tener que labrarse una vida quienes van a tener que generarse oportunidades

oportunidades fueran reales y les dotaran también de herramientas para competir en un mundo que se transforma a pasos agigantados que ya está transformado pero que sigue ese proceso

un mundo abierto esto en su acepción más positiva y un mundo cada vez más exigente también en el mercado laboral que obliga a que nos dotemos

y antes de entrar en consideraciones particulares quiero compartir con ustedes una serie de datos que son

no generan ninguna polémica en euskadi el treinta y ocho por ciento de las ofertas de trabajo exigen inglés

euskadi se ha convertido junto con madrid en la comunidad autónoma en la que hay un mayor porcentaje de ofertas de trabajo que exigen un idioma extranjero y esta cifra crece año a año no es un dato debatible sino que es una realidad objetiva

para pasado mañana entre ellos entre esos objetivos está que la mitad de los jóvenes de quince años puedan manejarse como usuarios independientes en la primera lengua extranjera

en inglés en europa este porcentaje está ya en el cuarenta y dos por ciento en el resto de españa en el veintisiete por ciento y en euskadi el propio consejo escolar vasco llegó a firmar en sus informes que la meta está muy lejana

revelan que el sistema educativo vasco se está quedando atrás en el aprendizaje de lenguas extranjeras sigo con los datos objetivos la red pública vasca no llega a la media del resto de comunidades autónomas en porcentaje de alumnos que estudian materias en inglés según detalla

el setenta y nueve por ciento de los niños de segundo ciclo de infantil de tres a seis años aprende inglés en el colegio euskadi no llega

quince hay nueve autonomías nada más y nada menos que nueve autonomías más la ciudad autónoma de ceuta con porcentajes superiores al noventa por ciento en primaria es decir los niños entre seis y doce años la enseñanza del inglés

en toda españa la red pública vasca en esta franja en este rango de edad ocupa el puesto número diez es necesario añadir el alumnado de colegios privados y concertados para mejorar este porcentaje y ascender hasta el puesto cuarto también ocupamos

entre los estudiantes de doce a dieciséis años es decir en secundaria la suma de escolares de la red pública y concertada no llega al quince por ciento de la media española

solo un trece por ciento de los profesores vascos están acreditados para impartir cursos clases en inglés para dar clase de inglés como ustedes saben en la enseñanza de nuestra comunidad autónoma se exige el nivel be dos

un título que han acreditado solo un trece por ciento de los profesores

si a los docentes de la red pública se les exigiera dar clases en inglés al mismo nivel que en euskera el ce uno únicamente el ocho por ciento tendría esa capacitación oficial el consejo escolar de euskadi

en los próximos cinco cursos lo que significa una oportunidad para revertir este mapa que les acabo de describir

para afrontar este inmenso reto yo

algo que creo que podemos seguro compartir todos el debate sobre la educación es un debate

es verdad el modelo educativo que unos y otros defendemos aunque tenga elementos de coincidencia es verdad que tiene una carga ideológica importante unos ponen el acento en unas cosas otros la ponemos en otra y es un debate que tendremos la oportunidad de abordar a lo largo de esta legislatura esperemos

despojarnos unos y otros de perjuicios y dotarnos de mucha generosidad y mucha altura de miras para que llegue a buen puerto pero

que es el de la materia de la enseñanza de un idioma extranjero que debe de estar despojado de perjuicios ideológicos y de apriorismos y es verdad también por continuar con esta sinceridad que nuestra comunidad autónoma tiene entre otras muchas singularidades una lengua propia una lengua particular

que el euskera sea una realidad y que el euskera

protegiendo y hay que seguir impulsando para que esa buena salud

de la sociedad como es por ejemplo el uso del euskera no solo de conocimiento

y no es menos cierto que el debate en torno a la educación en euskera ha estado también plagado de mucha confrontación y mucho debate político

poco edificante pero tenemos que hacer un esfuerzo por trascender también de los posos del pasado de estos debates para aceptar una realidad a la que no podemos ser ajemos porque podremos tener nuestros posicionamientos políticos particulares

de la educación particular pero hay una realidad que nos supera y es que o dotamos de la herramienta del conocimiento de la lengua extranjera del inglés en este caso a nuestros chavales y chavalas a nuestros jóvenes

un flaco favor les vamos a imposibilitar no solo el acceso al mercado laboral cada vez más complejo cada vez más competitivo y cada vez más exigente

sino que les vamos a imposibilitar la opción de que puedan relacionarse de que puedan acceder a un mundo que está ahí al alcance de la mano pero que se desenvuelve en inglés

que es lo que significa el conocimiento en este caso también de una lengua de una tercera lengua como es el inglés y lo que sería un profundo error

de esta lengua y por lo tanto la asunción de herramientas para competir en ese mundo global para tener una cultura más amplia más ancha para darles herramientas para que puedan

esté limitado a quien se puede pagar una educación en inglés esté limitado a quien puede permitirse el lujo o no lujo pero a quien puede permitirse por su nivel de renta

donde además del euskera y el castellano le van a enseñar inglés sería un profundo error

porque no seamos capaces de abordar este tema como realmente lo merece que quien pueda permitírselo ofrezca a sus hijos una educación en la que salgan con competencias en inglés y hoy la realidad hoy en el año dos mil diecisiete la realidad objetiva

es que solo quien puede permitirse hacer un esfuerzo económico dota a sus hijos del conocimiento del inglés solo quien hoy puede permitirse escolarizar a sus hijos en una educación privada o concertada o

la educación de sus hijos con clases extra escolares solo quien puede permitirse ese esfuerzo económico dota a sus hijos de la herramienta del inglés para competir en ese mundo que les he descrito cada vez más complejo y cada vez más competitivo

esos recursos le condenamos permítanme la expresión a que probablemente hable bien castellano probablemente hable bien euskera probablemente no hable ninguna de las dos bien

del inglés y esto es algo que por encima de nuestras posiciones políticas y partidistas debería de unirnos a todos revertir esta situación en otros lugares se está haciendo

la coexistencia de dos idiomas oficiales también en la educación entraña una dificultad introduce un elemento que nos obliga a esforzarnos y a desprendernos de prejuicios no hay dudas pedagógicas

sobre la posibilidad de introducir

en sus más altas exigencias o la coexistencia del aprendizaje profundo del euskera y el castellano no hay dudas pedagógicas sobre esta materia

lo que falta es la valentía política para abordar esto como se merece

queremos hacerles un planteamiento de ambición un planteamiento

a través de una proposición no de ley pero un planteamiento que se traduzca en que este parlamento se posiciona firme

ese convencimiento y esa decisión ambiciosa de dotar de esa herramienta

en la educación pública porque como les he dicho antes la concertada y la privada

por eso les pido el voto a favor de esta proposición no de ley y les pido que compartamos no solo el objetivo

sino las medidas que hay que adoptar para conseguir ese objetivo pasar de la retórica a los hechos muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

y de la última evaluación diagnóstica de euskadi dos mil quince fundamentalmente iguales a nivel de resultados

a pesar de ser en un caso muestra por modelos de alumnado de quince años y en otro

estos nos deben de llevar a reflexionar sobre la posibilidad o la pertinencia de efectuar cambios en los modelos lingüísticos de la enseñanza obligatoria

que mejor responde a la evaluación que antes he mencionado hay que tener en cuenta que es el que tiene la lengua de instrucción y familiar en euskera el resto de alumnado no logra alcanzar el mismo resultado

lortzea ari gara el tercer idioma como aquí se comentaba no tiene porque necesariamente ser el inglés consideramos que el centro cada centro debería de tener autonomía para poder elegir el tercer idioma que considera apropiado para

situemos y muy importante

por un modelo que respete un marco de mínimos para todos y todas tanto en porcentajes como en cuanto a perfil de salida y es en este punto donde todos los grupo parlamentarios que afortunadamente hoy la mayoría hemos llegado a un acuerdo

esto es consensuar un marco de mínimos con el que todas nos sintamos identificadas en definitiva autonomía dentro

además tenemos claro que el aprendizaje de cualquier idioma

es decir no aprender la lengua sino aprende cosas en esa lengua consideramos

es la metodología que se ha mostrado eficaz de cara a conseguir los objetivos

en definitiva desde elkarrekin podemos creemos que lo realmente importante es avanzar hacia escuelas sin segregación ni de carácter social ni lingüística tenemos claro que no queremos políticas educativas ni lingüísticas que excluyan eta batez ere

bien alrededor del ochenta por ciento de los niños y niñas del norte de europa hablan inglés en la escuela

la gran mayoría de las escuelas concertadas y la gran mayoría de las ikastolas trabajan materias utilizando el inglés como lengua vehicular la red pública aun no y está que necesita ese impulso la red concertada lleva su propio impulso

y todas lo están haciendo con las características diferenciadas de cada una de ellas lo que instamos al gobierno vasco es a implantar de forma progresiva y con carácter general la educación trilingüe a generar la educación trilingüe

para que todo el alumnado sea capaz de desenvolverse con competencia real en euskera y castellano y con una competencia suficiente en la tercera lengua en la lengua extranjera porque si no avanzamos en esta materia en el conocimiento del inglés no seremos competitivos

para reforzar la capacitación lingüística y metodológica de los docentes y esto además es un cumplimiento de los objetivos de la unión europea para dos mil veinte

sino que además es la competencia transversal

cada vez para más y por lo tanto nosotros no podemos permitir que nuestros alumnos de la educación pública por no poder acceder a estos bienes se vean en desigualdad de condiciones con otros a la hora de adquirir un puesto de trabajo de viajar por el extranjero en un mundo globalizado por eso año reiteramos la necesidad de no perder el tiempo no podemos perder el tiempo en esto porque mientras nosotros estamos parados

y la distancia se puede ir ampliando no podemos aceptar brechas lingüísticas ni entre redes ni entre centros educativos de la comunidad ni mucho menos entre la comunidad y el resto de comunidades y el resto de europa tenemos que avanzar y avanzar de forma que nos permita obtener los mejores resultados el inglés puede haber otras lenguas como decía la señora zabala es verdad pero el inglés es vital

que es la lengua del ámbito científico empresarial e intelectual y no puede ser que solo en los centros más activos

y sobre este tema además podemos hablar los socialistas con convicción nosotros pusimos en marcha el sistema educativo trilingüe que se inició en el curso dos mil diez dos mil once y en el dos mil once dos mil doce pero además pusimos en marcha lo siguiente

en sexto de primaria en algunas escuelas becas para estancias de cuatro semanas

para bachillerato secundaria y profesionales duplicamos el número de auxiliares en los centros educativos nativos de la lengua

llamado marco de educación trilingüe en el que los objetivos de la experimentación estaban claramente definidos para una mejora en el conocimiento del inglés o de otra lengua extranjera sin ponerle freno al avance en las competencias lingüísticas en euskera y castellano

buenos hemos hecho mucho en el tema del inglés y queremos seguir haciéndolo y por supuesto

porque consideramos que el euskera y el inglés no suman cero el sistema educativo vasco tiene carácter bilingüe porque las dos lenguas cooficiales son nuestras

y tenemos que mejorarlas e implantarlas pero con el progreso a su vez de la generalización del inglés el sistema en su conjunto está trabajando ahora mismo con una atención preferente al euskera y en un marco flexible donde se respeta la autonomía de los centros y la libertad de elección de las familias sabemos que la educación y la gestión del sistema educativo

pero eso no puede permitir que nos paremos el alumnado bilingüe a pesar de lo que algunos dicen tiene muchísimas más facilidades y posibilidades de aprender la tercera lengua sea esta el inglés sea esta el euskera o sea esta cualquier otra se confirma además que la lengua extranjera ha de ser objeto de enseñanza e instrumento para el aprendizaje de otras materias y se ha confirmado que el avance en el dominio del inglés no ha supuesto ningún freno en la progresión de las competencias lingüísticas en euskera y en castellano

que han sido impartidas en lengua extranjera por ello hay que dar un paso para extender gradualmente la enseñanza trilingüe a todo el sistema educativo vasco

porque vivimos en un mundo globalizado internacionalizado y nuestros jóvenes tienen que gobernar ese mundo globalizado y tienen que estar perfectamente preparados para hacerlo ya lo advertimos en su momento y así lo han confirmado por cierto los datos del informe pisa

una progresiva tendencia en el empeoramiento de los resultados ya observados en la edición del dos mil trece y el empeoramiento afectado a las competencias lingüísticas

y que se asuma como una herramienta elemental de trabajo al igual que se hace con las tecnologías de la información es preciso sobre todo en un país en el que por pequeños que seamos aspiramos con derecho a ocupar un lugar puntero en el panorama europeo e internacional

como elemento de modernización del sistema en su conjunto pero debe estar sostenido en una escuela que tiene entre sus funciones también la de mitigar las desigualdades y en una escuela bilingüe por tanto y como conclusión la lengua extranjera de ir a todos los centros educativos estén donde estén

euskadi ocupa el primer lugar del ranking los vascos y las vascas ocupamos el primer lugar en cuanto al dominio del inglés por encima de todas las comunidades autónomas

pero no partimos de la catastrófica situación que usted trata de trasladar murgiltze sistemei dagokienez euskadin egon badago

un modelo trilingüe a partir del proyecto lingüístico de cada centro bere horretan iruditzen zaigu esamolde horrek kontraesana duela

pues el esfuerzo va a tener que ser ímprobo porque entre el sectarismo de la señora ubera y el mundo feliz

en inglés resulta que todos los datos toda la información oficial no somos los primeros o sea no ha dicho usted que estamos en la cabeza no no somos los primeros los números uno en el conocimiento del inglés pero usted conoce algún colegio público de verdad usted ha visto por ejemplo

en el centro de san sebastián de un colegio público sabe usted cuánto dan por ejemplo de tres a seis años en inglés

no tienen elementos comparativos con otras comunidades autónomas como madrid castilla león o incluso galicia

exista una segunda lengua oficial me está diciendo de verdad en serio en esta cámara desde esta tribuna que somos los primeros en euskadi pero usted conoce la realidad de los colegios públicos en esta tierra

chavales de modelo educativo de tres a seis años cuánto inglés dan

cero señora berriozabal en el centro de san sebastián

cero usted sabe lo que tiene que hacer

esa oferta irse a la concertada o a la privada donde hay modelos bilingües y plurilingües pagando

es condenar a que solo quien se lo pueda permitir pueda educar a sus hijos en inglés eso es lo que están haciendo y quien no se lo pueda permitir quien no se pueda pagar la educación concertada o un colegio privado quien no se puede pagar extraescolares de inglés no pueda aprender inglés

con este mundo feliz en el que hablan señora ubera de verdad demuestre un poco más de cintura y más mirada al futuro ya está bien de patrimonializar el euskera ya está bien

debates que son sensatos y son positivos como es introducir

con intención sucia deje usted el odio no cierre la puerta al euskera pero de qué me está hablando en qué dialéctica en qué frecuencia se mueve usted de verdad en qué mundo vive porque en el real no yo le estoy haciendo un planteamiento que trasciende de esas etiquetas ni les he etiquetado a usted ni tampoco lo voy a hacer en este debate pero ya basta de esta ortodoxia ideológica

le resultará muy cómodo permanecer en ese espacio de confort no me cabe la menor duda pero

no digo que no le resulte útil pero tiene un recorrido cortísimo y sabe a quién no le resulta cómodo y a quién no le resulta útil a las familias

de verdad que habla de atender las prioridades de las familias pregunte usted a las familias medias vascas qué prefieren

si prefieren que sus hijos aprendan euskera y castellano o euskera castellano e inglés pregúnteles pregunte usted a quienes tienen escolarizados sus hijos en la educación pública a ver qué prefiere

pregúntele qué prefieren de verdad que me está hablando usted precisamente usted con su discurso con lo que le hemos oído aquí de verdad que me está hablando de libertad de elección por parte de las familias démosles la oportunidad miren yo creo de verdad lo he dicho en mi primera intervención y voy a intentar no elevar más el tono

preocupante preocupante algunos discursos y algunas posiciones numantinas porque

yo no dudo que se han felicitado y oiga muy bien para ustedes es muy cómodo el acuerdo

quizás para ustedes sí pero no para solucionar lo que les hemos descrito porque claro ustedes en el primer punto hablan por hablar de generalidades porque nosotros creemos que ya no estamos en el tiempo

de la acción de poner medidas para resolver un problema que es objetivo y que es un problema que tienen las familias que tienen los chavales vascos las chavalas vascas que están estudiando en estos momentos o lo que se van a incorporar al sistema educativo

pública porque mientras ustedes siguen mirándose el ombligo hay un mundo que sigue avanzando que evoluciona y que se transforma y que cambia a la que ustedes condenan a los chavales vascos a las rentas más bajas y al que no se puede permitir pagar una educación en inglés

conozcan el idioma que les va a dar oportunidades en ese mundo global por su ortodoxia y por su obsesión por mirarse permanentemente en el ombligo qué es esto de que incorporaran mejoras y avances significativos pero a dónde vamos con esto un nivel suficiente de inglés my tailor is rich

para incorporar profesorado con capacitación suficiente de inglés

forme a nuestros chavales y chavalas en la escuela pública señora ubera y luego ya el colmo

vuelven a insistir en meterse en la vida de la gente esto de medidas efectivas para la normalización lingüísticas de las actividades familiares extraescolares y la vida del barrio del municipio

pero dele la oportunidad para que en libertad hablen el idioma que le dé la gana y en este caso concreto deles la oportunidad para que si quieren hablar en inglés
lo hagan mire yo estudié en francés yo estudié en un colegio público amaitzen joan no tuve la fortuna

no tuve la oportunidad de estudiar en euskera desde chaval porque creo que daba tres horas a la semana en euskera afortunadamente eso se ha revertido y afortunadamente hoy nuestros chavales y chavalas salen de la escuela aprendiendo y sabiendo euskera y no tuve la oportunidad tampoco de aprender en la escuela inglés tuve que esforzarme después aprendí francés soy de irun oiga

a iparralde si señora ubera esta es la realidad el treinta y ocho por ciento de las ofertas laborales en euskadi se lo he dicho antes se lo voy a repetir porque me parece significativo
el treinta y ocho por ciento de las ofertas laborales que se han estado haciendo en euskadi eskerrik asko sémper jauna término señora presidenta exigen el conocimiento de inglés cuando alguien quiere

y buscar oportunidades fuera de aquí tiene que saber inglés no queda otra

es como si hace años el graduado escolar hay que saber inglés

de acuerdo es muy legítimo pero que sus gustos que su ortodoxia no

y desde luego el partido popular va a comparecer a él para intentar doblegar
sus actitudes cerriles muchas gracias señora presidenta eskerrik asko sémper jauna eskerrik asko

eboluzioa ikusten dugu que la enseñanza pública obligatoria

independientemente de las situaciones lingüísticas de las comarcas y del índice de euskaldunización de los progenitores

decrecen y se convierten casi en marginales hay que tener en cuenta que es muy importante

es decir el índice socio económico y cultural los altos índices de inmigración en esos modelos

y estas evidencias nos las indica el instituto vasco de evaluación e investigación educativa y tenemos que tener en cuenta que el actual modelo educativo

pero como veo que seguimos con la inveterada costumbre de este parlamento de escenificar las diferencias y cuanto más amplio es el acuerdo más se empeña cada grupo en poner en evidencia lo que nos separa en lugar de lo que hemos sido capaces de hacer en común

de sentido práctico yo estoy satisfecho con el acuerdo alcanzado y no voy a salir aquí a escenificar lo que me separa y diferencia de cada uno porque todo el mundo lo conoce no comparto la desconfianza de la señora ubera hacia que el inglés pueda ser una especie de amenaza para el euskera no es cierto es todo lo contrario como demuestran los informes los estudios y los resultados es una oportunidad evidentemente tampoco

el discurso un tanto catastrofista del señor porque puede ser que a mí tampoco me satisfaga plenamente el acuerdo que hemos alcanzado es verdad supongo que tampoco al pnv ni tampoco a elkarrekin podemos ni tampoco a bildu pero los acuerdos

hay que hacer un poquito de discurso verdad que no que lo entiendo pero creo que no se puede demonizar el acuerdo alcanzado

para conseguir lo que realmente trata de decir que es la progresiva y generalizada implantación del euskera en la enseñanza pública sobre todo porque es verdad coincido en que la red concertada y las ikastolas tienen un mucho mayor nivel

del inglés pero creo que es un paso importante el que hemos dado así que por favor no salgamos aquí cuando somos capaces de alcanzar un acuerdo en un tema tan trascendente para

como es el conocimiento del inglés y pongamos por una vez al menos por una lo que nos une en valor y no lo que nos diferencia eskerrik asko

edo gutxienez paper hori betetzen edo antzezten el señor sémper está fuera de la transacción evidentemente pero también fuera absolutamente de la realidad

que no es una encuesta que ha hecho la señora berriozabal en su mundo feliz euskadi

navarra sesenta y uno coma veintiocho cataluña cincuenta y nueve coma sesenta y cinco a partir de ahí madrid canarias cantabria

tres comunidades con dos lenguas oficiales no sé cómo puede usted todavía poner en duda la capacidad

cuarta lengua la capacitación idiomática siempre es mejorable evidentemente también la suya y la mía en todas las lenguas que dominemos pero de ahí a decir que somos un absoluto desastre los vascos y las vascas me parece que es mucho decir cómo puede decir que

que qué prefieren euskera o inglés desde cuándo son excluyentes el euskera y el inglés alguna vez se ha hecho usted esa pregunta sustituyendo euskera con castellano

si el castellano y el inglés son excluyentes sí señor sémper puede usted leer la transacción y verá usted lo que nos ha dicho me parece que

yo he escuchado hoy desde esta tribuna ha sido la suya la verdad es que

cosa que puedo entender que pretendiera algún otro planteamiento pero de ahí a decir las barbaridades que usted ha dicho pues me parece que hay un largo trecho zabala andereak uste dut gaizki

estamos hablando de crear espacios y oportunidades para que los niños y las niñas que no tengan opción de comunicarse en sus entornos más cercanos en euskera también puedan practicarlo fuera del horario escolar espacios y oportunidades no imposiciones berriro diogu